originado una crisis económica grave que está provocando el cierre de muchas empresas de todos los tamaños con las consecuencias que sobre el empleo tienen

en este escenario y creo que es clara y esta situación lo peculiar es que nos obliga a reproducir aquí hoy

sobre el papel de la empresa privada en la sociedad actual y el papel del gobierno en

por eso a raíz de la proposición de ley que hoy debatimos quizá deberíamos empezar por recordar que los cierres empresariales que se han producido y los que sin duda se producirán en el futuro porque los mercados empresariales los mercados punto son vivos y cambiantes

de la maldad intrínseca ni del insaciable afán de beneficios de los empresarios sino en algunos casos fruto de la crisis económica provocada por la crisis sanitaria

pero debajo de la propuesta que hoy debatimos hay un sistema de creencias muy peculiar pero muy conocido desde hace muchos años la creencia de que las empresas cuando cierran lo hacen o para ganar más dinero o para fastidiar a alguien la creencia de que los empresarios son un enemigo

pero en general la creencia de que la iniciativa privada siempre es sospechosa

delito flagrante que es que el mejor modelo económico está basado

la creencia de que las empresas de que la administración perdón tiene que intervenir en la gestión de las empresas privadas porque las únicas empresas buenas

no son capaces de gestionarse por su cuenta supongo que por su incompetencia natural

a autodestruirse y que por tanto hay que intervenir en ellas asesorándolas

aunque no quieran ni necesiten y si es necesario pues obligándolas o incluso comprándolas

de creencias irracionales responde a una concepción de la economía antigua desfasada y obsoleta que necesariamente lleva a la reducción del emprendimiento y por tanto del empleo al sobredimensionamiento de la administración pública y del gasto y a la estatalización de la economía

de su capital de su gestión como se desprende de la enmienda del grupo asociado al grupo proponente

nosotros recomendamos simplemente mirar alrededor con los ojos abiertos y ver cómo está la realidad empresarial y cómo es la realidad

ni grupos de capital riesgo que por lo visto no deben ser del agrado del grupo proponente sino una multitud de pequeñas y medianas empresas que son la base de nuestra economía

que si va bien dará trabajo riqueza para el país y por supuesto beneficios para ellos y que si no va bien

perderán su patrimonio su trabajo y su ilusión y todos conocemos la capacidad emprendedora

que ha sido sin duda el motor de nuestro desarrollo la familia que decidió poner un pequeño taller en eibar

ellos son con nombres y apellidos los que están a la base de muchas de las empresas que hoy se mencionan en la propuesta los mismos que fueron perseguidos y asesinados por eta

en las que han trabajado nuestros padres o nuestros abuelos esos son los empresarios que tenemos realmente

hoy desde aquí creo que merecen todo nuestro reconocimiento y en una situación como la actual especialmente porque lo están pasando mal y merecen y necesitan nuestro apoyo

ni nuestra desconfianza la realidad es que hoy vivimos un entorno de cambio continuo y acelerado crisis como la del covid pero ha habido otra la crisis económica anterior y otras que vendrán en el futuro

b ueno está claro que la pandemia del covid está provocando cambios a nivel local a nivel nacional y a nivel internacional y muchos de estos cambios se van a convertir en estables no son coyunturales

podemos diferenciar entre tres tipos de situaciones claramente distintas tenemos empresas que son competitivas que eran competitivas antes de la crisis cuyo mercado no ha sido afectado sustancialmente por la crisis del covid y que por lo tanto se espera que cuando pase la crisis vuelvan a ser competitivas y que a lo mejor solo necesitan ayudas como los erte o como

para adaptarse temporalmente que son empresas que tienen un diseño competitivo y adaptado a su mercado que repito no ha tenido cambios sustanciales pero hay otras empresas competitivas también antes

ahora han cambiado radicalmente con cambios que van a ser estables es decir que se van a quedar seguramente para siempre y estas empresas deben reducirse

podemos efectivamente sostenerlas con ayudas públicas durante

y luego tenemos también el caso de empresas que no eran competitivas antes que estaban ya con problemas

y que bueno pues la pandemia la crisis económica no ha hecho nada más que darle la puntilla y por lo tanto que morirán irrefrenablemente

provisionalmente y otras permanentemente todas seguramente van a tener que introducir

pero recordemos que el primer interesado en la supervivencia de una empresa es

es el primer interesado en su crecimiento y en el mantenimiento de la empresa y la realidad es que nadie mejor que las empresas saben

mejor que ningún asesor gubernamental entre otras cosas porque los que se juegan la pasta

por tanto en esta situación cuál es el papel del gobierno hombre lo que seguro

en una empresa que no es suya y decidir lo que deben hacer los accionistas con el dinero

el papel del gobierno entendemos que es incentivar el consumo y crear un marco normativo que impulse la actividad económica

y la protección social de los trabajadores afectados solo en situaciones excepcionales muy excepcionales diría yo está justificado que un gobierno tome parte de una propiedad

y por el contrario debe salvaguardar su papel de árbitro natural garante de los intereses públicos y de las reglas de la competencia lo cual no quita para que haya por un mecanismo o por otro algún sistema de vigilancia de cómo está evolucionando el sistema empresarial en

para detectar precozmente los movimientos naturales que se producen que afectan que al final terminan afectando siempre a los intereses públicos y eso por lo tanto

pero desde luego el papel del gobierno no es como se dice garantizar la supervivencia de las empresas

solo la garantiza el mercado su mercado que es una realidad viva y cambiante a la que la empresa deberá adaptarse continuamente

como gestión de salud es decir para garantizar la continuidad del resto de puestos de trabajo el mayor tiempo posible por tanto concluyendo en este momento de grave crisis económica creo que tenemos que ayudar a las empresas a mantener y generar empleo discriminando muy bien cuál es la situación de cada uno y cuál es la situación de su crisis debemos ayudarles a readaptarse a redimensionarse si hace falta

y que tenemos que generar para ellas un entorno atractivo porque sin eso no generaremos riqueza en euskadi gracias eskerrik asko

eta enpresa ehunaren galera saihestea batez ere industria sektoreetan y eso requiere en nuestra opinión

y sí de una política de intervención decidida en la economía obviamente ya sabe señor gil vegas que nosotros no estamos de acuerdo

con su exposición pero sí que hay una cosa que creo que en una ocasión

es importante eso de que algunas concepciones ideológicas consideran que las empresas cuando despiden

de los empresarios o de los propietarios de las empresas eso no es algo que diga la izquierda eso es algo que la derecha pone en boca de la izquierda constantemente

es que actúan determinados intereses y no hacemos una valoración moral sobre maldad

sino sobre cómo operan los intereses concretos porque el mercado no se autorregula solo porque los propietarios diseñan

diseñan estrategias porque ellos intervienen en el mercado

en este país y por lo tanto desde los poderes públicos sí nosotros pensamos que se tiene que intervenir en defensa del empleo es cierto que ciertas regulaciones y legislaciones algunas provenientes de la unión europea limitan

pero no es menos cierto en nuestra opinión que la política del gobierno vasco como la de otros gobiernos del entorno nunca ha sido la de aprovechar la capacidad

la política del gobierno vasco en nuestra opinión entiende las decisiones y el devenir de las empresas

a pesar de dedicarse millónes de euros de dinero público a través de diferentes programas y fondos públicos y semipúblicos al tejido empresarial

no ni tan siquiera existe una política de condicionamiento real de las ayudas y recursos públicos que llegan a las empresas

se entiende con razón la indignación de las y los trabajadores que muchas veces piden explicaciones al gobierno vasco sobre dinero público destinado a su empresa cuando les están despidiendo cada poco tiempo tenemos un ejemplo así en este parlamento no solo ahora con la crisis que tenemos encima

hace que las actuaciones del gobierno vasco lleguen tarde y mal cuando una empresa plantea un expediente de regulación de empleo o despidos colectivos o acaba en un concurso de acreedores por eso a nosotros pues la idea

nos parece positiva cada vez que escuchamos las noticias sobre despidos o cierres de empresas suelen ir acompañadas efectivamente de la palabra crisis empresas en crisis en ocasiones esas crisis son reales

que ni siempre se trata de crisis reales ni el hecho de que una empresa esté en una situación que podamos catalogar de crisis debería llevar necesariamente al planteamiento de los despidos

cuando se habla de empresas en crisis sabemos y sobre todo lo saben las y los trabajadores cómo suele acabar la historia con despidos el modelo empresarial capitalista hace sus ajustes básicamente

sobre las y los trabajadores y las razones no siempre se corresponden con una necesidad incuestionable para garantizar

de una empresa llama por ejemplo la atención que empresas que han sido consideradas estratégicas por el propio gobierno vasco en los últimos años que no han tenido problemas económicos sino todo lo contrario y cuya solvencia económica

estén acudiendo sin embargo de forma idéntica a despidos colectivos ante una situación coyuntural provocada por la pandemia alguna de estas empresas ya las mencionamos hace unos meses cuando desde elkarrekin podemos izquierda unida trajimos una proposición no de ley que fue rechazada por los partidos que apoyan al gobierno junto

pero después de aquel debate hemos podido escuchar a las plantillas de algunas de estas empresas en este parlamento

la última este lunes pasado pues

demostrando que la empresa y el grupo empresarial no solo han ganado mucho dinero durante los últimos años sino demostrando que las previsiones no eran malas ni a medio plazo

y que la viabilidad de la empresa no estaba en cuestión sin embargo pues ahí están en la cuenta atrás para la patada que

dos semanas con el expediente de regulación de empleo en su fase de consultas hablamos por lo tanto de despidos colectivos que solo se deberían permitir en caso extremo e inevitable sabemos que la reforma laboral de dos mil trece facilita de tal manera los requisitos para poder ejecutar esos despidos

sin ningún tipo de justificación económica las situaciones

pero en muchas ocasiones sabemos que se ha preparado el terreno en base a estrategias concretas para poder abordar y justificar los expedientes de regulación

bien asesorados por supuesto por los mejores despachos de abogados no es una cuestión de maldad

desde deslocalizaciones puras y duras a la simple búsqueda del abaratamiento del costo salarial adelgazando o subcontratando plantilla

lógicamente por malas gestiones o distintas estrategias en ocasiones también sale más rentable cerrar una empresa para abrir otra

a veces incluso con los mismos operarios lo cual requiere de una planificación

ingeniería para engañar a quien debe controlar esto y esto se hace esto pasa y no es tan excepcional en euskadi por eso es tan importante también distinguir de las situaciones de crisis real y otras situaciones que no responden a crisis

y para eso sería útil también el planteamiento que hay en la transacción

eh bildu y elkarrekin podemos izquierda unida muchas empresas vascas acuden también a otros países para producir menos dinero por menos dinero lo que antes se producía aquí

internalización desde luego esto el nombre que tiene es deslocalización un ejemplo reciente lo tenemos en matricerías deusto filial del gigante de la automoción gestamp que ha decidido cerrar bajo la excusa de que los productos aquí fabricados no pueden competir con los fabricados en otros lugares otro ejemplo es el de trenasa que aunque sea una empresa navarra es una filial de caf

porque sale más barato fabricar en polonia eso sí para cerrar dirán que la empresa está en crisis trenasa en este caso concreto y que la cosa está mal

ingentes cantidades de dinero público tanto el gobierno navarro en el caso de trenasa como del gobierno vasco en el caso

por eso es importante también que el dinero público vaya condicionado

aprovechando el debate que nos ha traído el señor casanova desde nuestro grupo en la idea

legislatura es profundamente injusto que empresas con importantes beneficios durante años despidan trabajadores de manera colectiva más aún cuando muchas

manera cuando una empresa tiene problemas económicos y se empiezan a plantear despidos bajadas salariales o directamente los cierres nadie excepto los trabajadores

los posibles beneficios y repartos de dividendos que esa misma empresa haya podido tener en otros momentos las vacas gordas son para los de arriba

aunque sean a veces reales son siempre para los de abajo

estamos hablando de empleo que como decía es un derecho y las autoridades públicas deben velar por él las empresas grandes pequeñas medianas hoy en día están absolutamente interrelacionadas entre sí

económicos y economicistas nosotros sí proponemos un modelo donde desde lo público se intervenga en la economía

los empleos y eso requiere determinadas intervenciones

en el mercado operan intereses privados y del mercado

dependen del mercado dependen los puestos de trabajo los empleos que son un derecho y por eso defendemos la intervención pública eskerrik asko hernández jauna

tenemos que agradecer hoy a los señores de bildu los proponentes y a los señores de podemos sus iniciativas en esta enmienda transaccional que han firmado parece ser que han encontrado la piedra filosofal ustedes van a conseguir que no haya paro que no haya despido

hablando ahora en serio el mundo en la empresa no es así y ustedes lo saben no existe per se un dogma tal que si las empresas caen o se van

cierran o se van por un claro motivo por un lado la crisis del covid diecinueve y por otro lado sus políticas de expolio fiscal que las hacen menos competitivas

hay que escucharlas y buscar puntos de apoyo entre sus objetivos sus necesidades e intereses y los de la región esa relación evidentemente no es fácil

por ello en vox apostamos por la creación de un protocolo independiente que sea capaz de dar cuenta con cierta objetividad de cuál es la situación real de la empresa de su viabilidad y de las opciones más factibles para evitar despidos los límites y los controles que ustedes proponen son la mejor receta para evitar que las grandes empresas se acerquen a nuestra región quién va a invertir aquí si les vamos a impedir

nadie quién va a invertir si cuando les vaya mal tenemos a los señores de bildu y podemos diciendo que se aguanten que bastante ganaron cinco años atrás

a nuestro país nadie y lo que es peor las pocas que quedan

a los vascos si conocen alguna multinacional que ante ese escenario que ustedes proponen eligen españa o euskadi como sede para instalar sus empresas

aunque cada vez evidentemente será más difícil ya que ahora son socios del gobierno de españa y le disputan también al pnv el liderazgo del mercadeo político

gobernar esperemos que no con estas propuestas que nos están trayendo unas políticas las suyas que generan pobreza y miseria unas políticas que convertirán a nuestra región en bolivia o venezuela lugares donde tanto aprecio les tienen los trabajadores y además donde los pocos que quedan no les tienen mucha simpatía

zituen el compromiso de este gobierno no está únicamente en recoger el testigo de lo que puso en marcha el anterior gobierno está en haber sido capaz de irlo adaptando para adecuarse a las necesidades

indudablemente la evolución de la pandemia y sus derivadas obligan a readaptarse a ajustar las medidas a las necesidades concretas sin tutelajes claro está pero poniendo a disposición del tejido económico de euskadi

ir adoptando medidas a fin de adaptarse ellos también

el gobierno de españa también ha puesto en marcha innumerables medidas que en algunos casos han sido nombradas por el señor casanova y no solo nombradas sino incluso ponderadas

indudablemente sincero en cuanto al reconocimiento del buen hacer del gobierno de españa un claro ejemplo de todo esto es sin duda

escasas semanas cuenta con dos millónes más que se suman a los veinte que ya estaban previstos desde abril un programa que ya se readaptó hace unos meses

decir un programa de apoyo a pymes extractivas transformadoras productivas de servicios técnicos relativas a la sociedad de la información y comunicación en definitiva a un espectro muy amplio de empresas que se han visto especialmente por esta crisis sanitaria y sus consecuencias un programa de urgencia que refuerza el motor económico de euskadi y que también sienta la base para iniciar el tránsito

a los retos industriales y tecnológicos que sin duda vendrán un programa que forma parte de una estrategia conjunta de un trabajo conjunto transversal

del gobierno de apuesta firme por el empleo y la reactivación económica bideratu al igual que el resto de políticas que forman el programa de acción de este gobierno mejorar la calidad del empleo impulsar el emprendimiento y el apoyo

a las micropymes y a los autónomos y que deben facilitar también el acceso a un empleo a las personas desempleadas con mayor dificultad de reinserción en la vida laboral esos son

prioritarios de este gobierno además por supuesto de otras en muchas relativas a esta cuestión pero que además de eso

del departamento de trabajo y empleo también afectadas mencionadas en esta iniciativa

las políticas dependientes del departamento de trabajo y empleo lideradas por

ya están en marcha políticas que refuerzan el papel de la economía social en el tejido productivo de euskadi

y el impulso de un modelo inclusivo participativo de los trabajadores y trabajadoras en la empresa vasca como ya lo hiciera la anterior consejera maría jesús san josé con la declaración

y más justa de esta crisis que ya está habitando con nosotros por eso seguiremos aplicando políticas orientadas a la búsqueda de una mayor calidad en el empleo en términos de estabilidad laboral y condiciones de trabajo

de las por las personas de proyectos de vida dignos eso ya está en marcha

gobierno políticas que garantizan la cualificación profesional y la adecuación permanente de competencias como un elemento clave de la competitividad y la sostenibilidad empresarial

progresivo de la negociación colectiva como instrumento básico para la distribución de la riqueza colectiva y la extensión del bienestar que avanzan

el uso de la flexibilidad interna negociada en el seno de las empresas que se dotan de instrumentos eficaces de articulación de los marcos generales con los acuerdos en las empresas para permitir la adaptación de aquellos a las necesidades específicas de esta que se desarrollan en el contexto de un diálogo social

de base amplia que aspira a integrar en su seno a todos los agentes sociales sin excepción para avanzar hacia un modelo de concertación de las políticas públicas que es un elemento de identidad propio de euskadi

como objetivo central la promoción de la igualdad efectiva y mujeres para incrementar la corresponsabilidad garantizar la equidad y activar el talento sin sesgo de género

y el bienestar de las personas en el ejercicio de sus actividades laborales que son capaces de crear condiciones objetivas y herramientas legales y convencionales que favorecen el incremento de la participación de las personas

y que se orientan con carácter general a favorecer esa sin duda en definitiva eso también es cogobernanza es la colaboración entre el gobierno de euskadi y el gobierno de españa también con las diputaciones también

pero también con las empresas también con los agentes sociales que todos desde la unidad también tienen una corresponsabilidad junto con este

para superar este momento tan delicado en definitiva

de un esfuerzo colectivo como sociedad que nos permita recuperar el pulso económico productivo y laboral haciendo posible una salida de esta crisis

sin dejar a nadie atrás y sin perder el rumbo hacia un modelo de futuro

de lanza de la economía y el empleo europeo eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eta ni yo hago el mío mi trabajo un trabajo de defensa del gobierno

tengo que analizar lo que nos plantea y analizándolo y con carácter general no exclusivamente esta iniciativa le diría que valoro su trabajo cómo utiliza sus iniciativas cómo las cuida y las protege me gusta cómo titula cómo pone el foco en una determinada cuestión

elaboradas justificaciones en las que crea una realidad donde hace aparecer seguramente porque existe evidentemente claramente una necesidad

de justificación a parte dispositiva y por último cómo cierra con esa parte dispositiva donde nos propone la solución

para cubrir aquellas necesidades como ven no tengo más que admiración hacia su trabajo ahora haciendo un análisis más concreto de esta iniciativa

pero a mi juicio debería titularse algo así como la falta de atención a empresas en dificultades una mentira vestida de verdad

y me explico y en referencia a las ideas de su justificación nos dice el cierre de una gran empresa

tractor de estas empresas afecta a municipios incluso a comarcas enteras

la defensa del empleo la supervivencia de las empresas afectadas por situaciones de crisis deben ser una prioridad para las instituciones el empleo es un derecho que deben defender los poderes públicos cierto si el empleo está ligado a la actividad industrial los beneficios son muy diversos las condiciones laborales en general son mejores

cierto en estos momentos en términos económicos nos enfrentamos a una situación muy difícil y se refiere a la destrucción de empleo provocada por la pandemia cierto y terminar escribiendo y le cito ya que este es el objeto

como en la fábula esto es falso es una mentira vestida con las ropas de la verdad de anteriores afirmaciones ciertas

una el gobierno vasco se inhibe y otra el gobierno vasco improvisa la primera patita se inhibe el gobierno vasco se pone de perfil suele decir usted

hacer de mero espectador hacer de público tengo claro que en esta cuestión difícilmente llegaremos a un acuerdo lo que para usted es ponerse de perfil o inhibirse para mí es una actitud proactiva e increíblemente comprometida

que resultan críticos la innovación la internacionalización la inversión generadora de empleo la financiación la cooperación la formación

herramientas gestionadas proactivamente que permiten a estas posicionarse en el mercado de forma más competitiva no obstante en ocasiones y como aquí se ha dicho y a pesar de todos los esfuerzos de todos los esfuerzos de todas las personas

son casos que en periodos de contracción de la economía como el que hoy vivimos pueden llegar a ser numerosos este tipo de situaciones son atendidas por el gobierno vasco fundamentalmente desde dos ámbitos competenciales el de trabajo que atiende de los procesos de

vigente la legalidad la oportunidad la proporcionalidad de las medidas propuestas por las empresas

desarrollo económico sometido a severas limitaciones de actuación por la normativa comunitaria los casos de empresas con dificultades de carácter coyuntural derivados de problemas sobrevenidos de carácter financiero comercial o productivo con una incidencia

son sistemáticamente analizados por este gobierno a fin de determinar si es posible acometer alguna actuación de carácter financiero

que permitan favorecer la solución en estos casos de empresas en los casos de empresas con problemas de carácter estructural el gobierno requiere necesariamente la presentación de un plan sólido de reestructuración y recomposición de las condiciones

con una importante apuesta económica por parte de los empresarios y con acuerdo de la parte social quizás desde fuera puede parecer una cuestión subjetiva

el mío pero para mí realmente sinceramente no es así desde mi óptica para mí el esfuerzo de este gobierno

con centenares de reuniones y contactos a todos los niveles

entidades financieras otras instituciones realmente un gran esfuerzo y eso no es ponerse de perfil la segunda de las patitas falsas el gobierno esta acusación suya al gobierno en su iniciativa en su justificación sí que a mi juicio es objetivamente más fácil de demostrar se desmonta yo creo documentalmente

el concreto objeto de su iniciativa creación del protocolo también lo llama guía de intervención institucional

han presentado sistemáticamente sus líneas básicas de actuación donde se recogen claras referencias a esta cuestión que hoy nos plantea

también el gobierno en multitud de ocasiones nos ha presentado planes fondos programas proyectos que impactan en elementos básicos del objeto del debate de hoy

pero me gustaría destacar un momento un momento muy didáctico comisión de desarrollo económico del trece de noviembre de dos mil diecisiete comparecencia de la sailburu

en empresas en dificultades ese día que usted estaba presente se proyectó este esquema no sé si se ve

que es un mapa esquemático de las actuaciones sistemáticas que este gobierno realiza en empresas en dificultades ese día se nos demostró cómo este gobierno nunca ha improvisado

es posible que también ese día usted tuviese la ocurrencia esta que hoy nos trae señor casanova las herramientas técnicas y jurídicas

han estado preparadas siempre para terminar a modo de resumen usted en su parte dispositiva después de su justificación nos plantea

una pequeña incompleta y mala copia

evidentemente qué quiere que le diga ante su floja copia y la auténtica acción del gobierno me quedo con la segunda por todo ello nosotros

en nuestro texto de enmienda que continúe facilitando la reestructuración de empresas en dificultades a través del refuerzo del programa bideratu

y el apoyo a la realización de inversiones necesarias para abordar las transiciones tecnológicas fundamentalmente digital y energética en las que estamos inmersos también complementado

recolocación de las personas trabajadoras le décimos al gobierno que siga impulsando el modelo de relaciones laborales a través de la participación de las y los trabajadores en la empresa su vinculación y la mejora de la transparencia dando así respuesta efectiva a la proposición no de ley

de empresa vasca en consonancia con lo establecido en la declaración de oñati por todo esto apoyaremos nuestro texto

porque este viejo profesor no sabe lo que es el neoliberalismo conocemos el liberalismo pero nunca oí a nadie utilizar el concepto de neoliberalismo nada más que para ofender

dicho eso decir me gustaría una respuesta pero como no va a ser posible hoy igual en otra oportunidad

sí que me gustaría aclarar cuatro o cinco cositas una de ellas es parece que tenemos un problema con el concepto de lo público privado nos gustan las escuelas públicas no nos gustan las escuelas privadas nos gustan las empresas públicas

pero si no no cuando una empresa privada hace una contratación numerosa de personas eso es un asunto privado cuando hace

perdonar también aquí tengo un pequeño problema

se apuesta por rescatar de empresas pero a la vez

no les dejamos que se redimensionen no les dejamos que se adapten a los mercados que es lo que verdaderamente garantizaría su supervivencia bueno tampoco lo entiendo

el hecho de que las empresas diseñen estrategias y tengan intereses son la prueba por la cual debemos desconfiar de ellas y reconozco que sí debo de echar mano de mi afán pedagógico para explicar

algo básico y es que las empresas rediseñan estrategias o diseñan estrategias

no contra nadie que no sea la competencia y que esto es lo que tienen que hacer que esto es lo que se espera de ellas y es

a las empresas no les interesa creo que está ya claro despedir empleados

decir a las empresas les interesa sobrevivir y captar talento y crecer

reducen plantillas es porque no les queda más remedio no lo hacen por ningún tipo de placer

del talante pedagógico estoy de acuerdo en que pueda haber en el mercado empresas que hagan trampas por ejemplo

maniobra que está prohibida legalmente porque no todas las empresas son buenas pero es que no todas las empresas son malas

efectivamente en las empresas como las personas hay de todo y lo que sí que tenemos que tener es una regulación que ya existe muy clara sobre lo que la empresa puede hacer y lo que no y hay que procurar que se haga una regulación que sea atractiva

en el mercado internacional vuelvo a tirar del carácter pedagógico para clarificar que internacionalización y deslocalización

son conceptos muy distintos y por último

estoy de acuerdo compartimos dos objetivos un objetivo básico que es el de crear empleo estamos todos de acuerdo en lo que parece que discrepamos claramente es en la forma de conseguirlo y estoy de acuerdo en que no conseguimos crear empleo

en su gestión y estoy de acuerdo completamente en que debemos de recolocar o de ayudar a la recolocación de las personas que son afectadas

estamos de acuerdo pero esto no es incompatible es más es complementario con las acciones de protección a los mercados y con las acciones de incremento de la competitividad que además

cuando habla de utilizar el término neoliberalismo en sentido peyorativo no bueno es un debate

nosotros no estamos de acuerdo con esa ideología con esos conceptos y ya está si a usted le parece que eso es peyorativo bueno es que esto es un parlamento esto es la política entiendo que aquí estamos para defender

y yo entiendo lo que usted dice y lo único que le reprocho en muchas ocasiones es que pongan en boca de la izquierda cosas que la izquierda no ha dicho

que los empresarios sean malos per sé la izquierda lo que dice

y que nosotros no compartimos que las empresas solo despiden cuando no les queda más remedio no lo compartimos porque a veces despiden porque viene bien

en unas ocasiones reprochables desde un punto de vista incluso ético en otras no tanto pero sí reprochables desde un punto de vista ideológico en el sentido de que producen

y nosotros defendemos que ante eso la capacidad de intervención de los estados de los gobiernos

porque tienen que defender los puestos de trabajo y en ocasiones pues eso puede entrar en contradicción con intereses particulares de empresas muy bien nosotros defendemos

el interés general en este caso de la sociedad vasca y pensamos que la intervención es positiva y no hay un lío entre lo público y lo privado no sé

y lo tenemos claro y cuando décimos que hay que intervenir hablamos también

etcétera porque el modelo que no compartimos es el modelo que se basa básicamente

un poco la posición del gobierno vasco o la política del gobierno vasco que dice el señor aiartza que

para ayudar a la competitividad de las empresas en innovación etcétera pero claro

en los mecanismos que funcionan en el mercado y que producen esos despidos con los que nos encontramos en multitud de ocasiones que no son inevitables y eso es la política que nosotros

sí defendemos es decir los recursos públicos si se utilizan para fomentar la competitividad de las empresas para ayudar a las empresas

tienen que tener unas garantías de que detrás de eso haya el mantenimiento de los puestos de trabajo que el interés general en nuestra opinión respecto a las empresas es que generen riqueza

y que haya reparto de esa riqueza porque se pone en cuestión desde un punto de vista ideológico el tema de las intervenciones o los rescates

hoy aquí es verdad que al único que le he oído palabras realmente frontales contra este modelo

sobre los rescates multimillónarios que se hicieron a la banca hace unos años en este caso por parte del estado

no sé eso es intervención pública desde luego fue un montón de dinero público que fue a los bancos

los bancos los gestores de los bancos efectivamente demostraron como usted dice

por eso provocaron una crisis de escala mundial la anterior crisis que tenemos mire sí las empresas son las que mejor saben cómo diseñar su futuro

pero igual tenemos también un concepto diferente de qué son las empresas en nuestra opinión

de las empresas son los que mejor saben diseñar el futuro de las empresas pero las y los trabajadores no son los que deciden el futuro de las empresas

control social por eso sí defendemos ese modelo esta semana lo demostró muy bien aernnova el comité de empresa de aernnova en la comisión

detrás de las decisiones de la dirección había intereses concretos que no son maldad
pero son intereses que van a dejar en la calle a gente eskerrik asko hernández jauna mistoak

eskerrik asko mahaiburu andrea efectivamente cuando estamos hablando de cuestiones de este calado hay muchas veces que incluso

porque es una cuestión que repercute de una manera muy frontal a la sociedad y que muchas veces incluso en nuestras propias fórmulas ideológicas

dé solución a esta cuestión creo que en esto también tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta y no tener siempre la cerrazón ideológica que únicamente

lo tenemos en el intento de superar esta crisis por parte de todos

y de todas indudablemente el plan de rescate que ha venido de europa

del trabajo conjunto de una conjunción de intereses por parte de los diferentes estados con un objetivo común que es superar esta situación evidentemente fruto de la negociación de la búsqueda de un acuerdo de la mano tendida pero sobre todo de la confluencia desde diferentes ámbitos incluso ideológicos intereses de los diferentes estados de la conjunción de un punto que nos haga más fuertes a todos y en este sentido creo que hay que poner muy en valor la representación el papel de la representación española en esa negociación porque va a ser fundamentalmente clave para que desde las diferentes comunidades autónomas y desde el propio estado fruto de todo lo que va a venir de esa negociación poder afrontar esta situación de manera muchísimo más

no le niego su buena voluntad porque además me la creo es decir

ninguna mala fe leyendo su iniciativa se mire por donde se mire indudablemente es una iniciativa de buena voluntad pero que creo que en muchas ocasiones excede de lo que compete al propio gobierno es decir el gobierno no puede ser responsable de todos y cada uno de los despidos que se producen en euskadi puede ser

en tanto en cuanto tiene que poner en marcha instrumentos que ya los tiene instrumentos de protección social que permitan que esas personas que se han quedado desempleadas no se queden desamparadas es una

no puede ser responsable de todos y cada uno de los despidos que se producen en euskadi como no puede ser corresponsable del devenir de todas las empresas de euskadi es decir creo que

de intervencionismo extremo excedería incluso de las propias competencias

tener permanentemente al gobierno poniendo el foco en las empresas

una fiscalización extrema sobre sobre su día a día yo entiendo que hay elementos y pautas de control de seguimiento de reorientación incluso

hacen que este gobierno de alguna manera fiscalice controle y reoriente en muchos casos distintas políticas y distintas actitudes precisamente

la economía en euskadi pero desde luego no creo que ese modelo de intervencionismo extremo ni sea viable ni sea incluso recomendable el gobierno lo que puede hacer es acompañar acompañar a las empresas facilitarles

por ejemplo que también poniendo capital en determinadas empresas empresas que por cierto también tendrán que aportar capital correspondiendo

facilitando otro posicionamiento en el mercado facilitando una mayor y mejor internacionalización a través de instrumentos que ya tiene puestos en marcha el gobierno

la modernización la mejora de las infraestructuras de las empresas para que sean

un trabajo transversal entre sus diferentes departamentos y por supuesto un trabajo transversal también entre instituciones y también entre los diferentes agentes sociales

las bases en forma de políticas ya están en marcha no de ahora

a través del diálogo con los agentes sociales y como decía el trabajo transversal para irlas adaptando en función de la evolución de esta crisis de esta situación que desde luego
ni va a ser corta ni desde luego va a ser ligera de soportar eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea de este debate sacaría una primera conclusión de conjunto creo que es una cuestión que nos preocupa a todos creo que se está evidenciando y una forma de evidenciarse está siendo el tono el buen tono entonces considero

subrayarlo iba a hacer una en este buen tono iba a hacer una valoración sobre el texto con lo cual había hablado de mala copia hablaré de no buena copia no buena copia y este texto transado a mí me parecía no buena copia de una no buena copia con lo cual ustedes lo que han conseguido con su transacción es empeorar a mi juicio el planteamiento inicial he trabajado con dos ideas iniciales la actitud proactiva

que tiene el gobierno en esta cuestión y luego la acción sistemática y planificada y señor casanova no era solo una transparencia eran muchas más

revise esa comparecencia en cualquier caso esas transparencias o esas proyecciones lo que

un mapa de esa acción sistemática del gobierno que el gobierno realiza en el caso de las empresas

una tercera idea nos decía usted también

pero en cierta manera se contradice yo entiendo que se contradice porque dice esto pero luego nos hace un planteamiento casi de checklist de comprobar un listado

es inmensa debe atender a cuestiones productivas comerciales financieras de gestión de talento de suelo de herramientas de programas de problemas medioambientales de problemas sanitarios

y usted nos plantea reducirlo a un seguimiento en un mero listado a mi modo de ver a mi modo de ver a mí no me parece un planteamiento del todo serio

y lo práctico una cuarta idea que nos traía aquí ahora después de haber hablado de estas cuestiones más teóricas una cuestión práctica

dentro de una empresa en dificultades y es muy duro vivir dentro de una empresa en dificultades no sé si usted ha vivido

para una empresa en dificultades hay una cuestión que es tremendamente dura que es la visualización la visualización de empresa de estar en dificultades hacia fuera no es tremendamente duro

acarrear ese reconocimiento para una empresa es muy duro es muy duro esta es una cuestión tremendamente práctica

a toda la teoría que desarrolla fundamentalmente a ese planteamiento de la acción

otra idea la idea de actuar con discreción la idea

yo creo que es esencial en cualquier caso y para terminar y siendo positivo creo que algo hemos avanzado más que en el tono no hace tantos

no voy a hacer un plan anticrisis porque no sirve para nada bueno hoy usted nos trae una pequeña incompleta y no buena copia de la acción sistemática y proactiva que este gobierno realiza yo lo considero sinceramente un avance eskerrik asko

pensamos que el modelo el modelo que está implementado en estos momentos en tolosaldea es el ejemplo

desde la sanidad pública de lo que no se debe hacer desde el gobierno vasco pensamos que es uno de los bueno de los ejemplos más claros que podemos tener

de cómo desde lo público desde la sanidad pública pues se favorecen intereses privados pensamos que este modelo de tolosaldea evidencia bien en esto nosotros estamos de acuerdo para tolosaldea

realmente público porque no lo tienen tienen el modelo contrario tienen un modelo donde desde lo público ponemos el dinero eso sí

pero desde un ámbito privado y muy concreto además

los servicios que se deberían ofrecer desde la sanidad pública y lucrarse con ello ganar un dinero con ello nosotros no compartimos ese modelo

ese modelo o ambos modelos diferentes contrarios es verdad que responden también en este debate a posiciones ideológicas pero ese modelo tiene una serie de consecuencias

y lo vienen denunciando muchas y muchos vecinos desde hace años

de las que las propias y los propios vecinos vienen denunciando hace años y además organizándose peor servicio

peores condiciones para las y los trabajadores que tienen que dar los servicios de sanidad

la clínica privada la asunción y

que es que una empresa con intereses particulares gana dinero prácticamente exclusivamente de lo público y nosotros pues no estamos de acuerdo en absoluto

con ese modelo hace muchos años como decía

contra este modelo y reclamando tener un modelo público nos parece una reivindicación absolutamente justa y además una de las cosas que dicen

es en otras comarcas parece que el modelo es diferente

y llevan razón nosotros pensamos que el gobierno vasco no da en estos momentos todavía las garantías y por eso no hay un acuerdo por nuestra parte y ayer vimos el mismo debate en juntas generales de gipuzkoa el modelo no nos da garantías a quienes defendemos que

realmente público no nos da garantías de que esto vaya a ser así en el futuro y no solo porque no se incluyan que también partidas concretas para

los próximos presupuestos para la puesta en marcha

de diferentes maneras de momento pues se habla de un plan funcional y nosotros pensamos

público para tolosaldea necesitan garantías de que el compromiso del gobierno de que el objetivo del gobierno

durante muchos años para acabar en un modelo realmente público y no tienen garantías y desde luego a nosotros la gente o nuestra gente que lleva participando muchos años también en ese movimiento

no nos perdonaría en estos momentos que no fuesemos

en ese sentido nosotros lo que le pedimos al gobierno vasco que sea claro que les diga a

si está dispuesto a que el futuro de la sanidad pública en tolosaldea sea realmente una sanidad pública es decir donde no haya

servicios que se presten a través de las empresas privadas porque además en el caso de tolosaldea

paradigmático cuyo director propietario pues se mueve muy bien con las administraciones públicas y se mueve muy bien a la hora de manejarse y defender sus intereses el señor gómez montoya ya ha dicho en

para él el mejor modelo sanitario es el modelo de titularidad pública y de gestión privada bueno claro

cómo no le va a parecer el mejor modelo no solo vive de eso se lucra de eso es normal que a él le parezca el mejor modelo a nosotros desde luego no nos parece el mejor modelo pensamos que a la administración pública del gobierno vasco no debería parecerle

el mejor modelo el señor gómez montoya me voy a referir también otra vez a él

particulares y nosotros pensamos que no se debe permitir que siga este modelo donde algunos se benefician del dinero público

para sus negocios privados el señor gómez montoya también fue parte de la propiedad de la clínica el pilar en donostia

unos años que curiosamente cuando cerró podíamos leer en toda la prensa que cerraba porque se habían desplomado las derivaciones

venía de la sanidad pública también habría una parte del negocio privado que es legítimo buscan sus clientes es la única clínica privada a la que yo he ido en mi vida a la clínica

cuando íbamos a tener a nuestra hija mayor pues se nos ocurrió que queríamos estaba de moda aquello de las ecografías

vimos la ecografía estupenda con perspectiva histórica tal vez una chorrada pero aquello

legítimo pero la mayor parte del negocio se sustentaba de las derivaciones públicas que podría debería darlo la sanidad pública que es el modelo ese es el modelo al que nosotros llamamos realmente sanidad sanidad pública lo digo para distinguir los dos modelos

porque este debate es sobre tolosaldea pero es un debate también sobre modelos en la sanidad para poner sobre la mesa pues que hay intereses privados que actúan y que se benefician del dinero público

y además cerró no sin sino en nuestra opinión también dar un pelotazo porque aquello estaba en unos terrenos

supuestamente se iban a ir a otros terrenos a cambio parece ser que se recalificaron la clínica no se fue a ningún sitio cerró ahora allí hay un solar

unas casas no sé si de lujo pero desde luego bastante caras y también la misma persona que está

en otra clínica en donostia pues que ha intentado o están intentando están en ello también influir en los planes urbanísticos

un hotel un gran hotel no y por lo tanto a donostia desde tolosaldea porque quería evidenciar que

y los problemas que ha generado y las protestas que hay contra ese modelo

en el que lo público pone el dinero y hay intereses privados

y si el gobierno está de acuerdo en revertir ese modelo nosotros estaremos de acuerdo con el gobierno pensamos que en este momento el gobierno no es no son esos sus objetivos bueno veremos

si esos son sus objetivos si son objetivos compartidos o no en este momento desde luego no creemos que sea así

no ha sido un asunto pacífico y ha estado lleno de incertidumbres a lo largo del tiempo

les diré que en dos mil once cuando el entonces consejero de sanidad y consumo rafael bengoa

reorganización sanitaria de la comarca ya ponía fecha y decisiones de este parlamento sobre la mesa que eran orientaciones y pautas que se habían seguido en un importante trabajo de determinación de la senda a seguir en el ámbito sanitario

han sido varios los hitos que hay que poner de relieve para entender este asunto el primero que en marzo de dos mil siete por el debate de una iniciativa socialista se aprueba por unanimidad una enmienda transaccional que consistía en que presentase el gobierno en ocho meses

desde el sector público teniendo en cuenta todos los recursos

un estudio propuesta de tres alternativas de planificación y organización sanitaria y en dos mil ocho el parlamento vasco este parlamento vasco opta por la tercera alternativa por la tercera opción en dos mil diez tras un proceso de reflexión se plantea

que adapta esa opción esa tercera opción de dos mil ocho de la integración de los recursos asistenciales públicos y privados decisión del parlamento vasco a las nuevas estrategias del departamento en octubre de dos mil once se cumple

por la que se solicita la presentación de un proyecto para la integración asistencial en tolosaldea que tenga en cuenta los trabajos realizados hasta la fecha

privada y que garantice en todo caso el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores del ambulatorio de tolosa

de esta cámara no son ocurrencias de agentes externos decisiones de este parlamento de aquí que el consejero bengoa y su equipo

que hubiese continuidad de cuidados entre la atención primaria y la atención especializada y también con los servicios sociales y sociosanitarios responsabilidad de la diputación foral en la comarca equiparando

al resto de comarcas de gipuzkoa y se planteaba el desarrollo de nuevos servicios en la clínica la asunción con un concierto mucho más resolutivo yendo a un modelo de financiación basado en la exigencia de resultados a la clínica y homologable al modelo de financiación existente en los contratos programas con otros hospitales comarcales

se constituye la osi tolosaldea describiéndose sus características y señalándose su complementariedad con la asistencia hospitalaria que se prestaba por los servicios correspondientes del hospital de carácter concertado

en los términos establecidos en el concierto formalizado entre el mismo y el departamento de salud de la comunidad autónoma y los socialistas vascos nos hemos

en los siguientes términos siempre hemos hecho pública nuestra posición por una asistencia sanitaria universal pública gratuita y de calidad para toda la ciudadanía vasca y española siempre hemos solicitado medidas para garantizar la asistencia sanitaria en la comarca de tolosaldea en las mismas condiciones de calidad

homologables al resto de las osi que hay en euskadi

para analizar la oferta sanitaria y continuar mejorándola y ante el debate que hoy tenemos

en el acuerdo de gobierno firmado el treinta de septiembre entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

donde se expresa el compromiso del gobierno para reforzar la salud pública de modernización y adecuación de instalaciones y equipamientos sanitarios indicando que se procederá a la aprobación de un plan específico de mejora y modernización de instalaciones y equipos sanitarios para toda la legislatura este plan contemplará entre otros la construcción de un centro de alta resolución en el municipio de tolosa

aprobado el pasado trece de octubre y que desarrolla el acuerdo de gobierno en el eje segundo

y en la iniciativa uno sobre aprobación de un plan general de mejora y modernización de instalaciones y equipos sanitarios que contempla expresamente la construcción

y nos basamos en las respuestas que por escrito y de forma oral

en las que se explicita por un lado que un centro de alta resolución es aquel donde se pueden resolver procesos diagnósticos y terapéuticos complejos

estando pendiente la definición de la cartera de servicios y que el proceso comenzará con la elaboración del plan funcional y del proyecto de construcción así como su expresión presupuestaria no hay un cronograma definido más allá de la redacción de ese plan funcional y del proyecto de construcción para dos mil veinte dos mil veintiuno

no siempre han sido homogéneas sobre la estructura sanitaria de la comarca han ido desde la incorporación de la clínica la asunción a la red pública a la construcción de un nuevo hospital o a la conversión de la clínica en una estructura a ofertar

y lo que hoy está claro y consta en el acuerdo de gobierno es ese compromiso del gobierno vasco de construir una infraestructura sanitaria pública que no tiene aún determinados

a la osi tolosaldea en su ámbito territorial de ahí la necesidad de elaborar un plan funcional como primer y fundamental paso para determinar los servicios asistenciales que se desplegarán en la osi de tolosaldea

que se está valorando la necesidad de contar con un centro de capacidades diagnósticas que incluya radiología convencional consultas externas de especialidades hospitalarias

y la adecuación del hospital de día así como la petición de un hospital convencional todo todo dependerá por tanto de ese plan funcional que se realice para determinar las características y servicios de esa infraestructura pública y los socialistas vascos desde nuestro compromiso por una sanidad pública universal de calidad y gratuita en euskadi

firmado por nuestro partido hemos presentado una enmienda conjunta con el partido nacionalista vasco que trata de mantener garantizada esa asistencia sanitaria pública universal y de calidad de la ciudadanía de toda la comarca de tolosaldea en las mismas condiciones que el resto de las osi integradas de euskadi

para poder elaborar cuanto antes ese plan funcional y poder concretar esos recursos servicios y la infraestructura sanitaria pública que resulten más adecuados y que respondan

asistenciales detectadas con el objeto de seguir mejorando

proponemos en nuestra enmienda que en la elaboración de ese plan funcional se tengan en cuenta criterios técnicos sanitarios criterios de población criterios territoriales criterios de organización

y los recursos económicos financieros disponibles en cada momento y por último y en aras a la total transparencia y con el objetivo de poner en conocimiento de esta cámara ese plan funcional instamos al departamento de salud a que lo presente en la comisión de salud del parlamento vasco tan pronto esté finalizado hemos querido dar un paso más avanzar

posible acuerdo y por eso ofrecimos a euskal herria bildu tanto el grupo nacionalistas vascos como socialistas vascos una propuesta de transacción que concretaba más que especificaba más y planteábamos que en los próximos presupuestos se incluya

y concretar esos recursos y servicios del hospital público de tolosaldea planteábamos también que se tenían que tener en cuenta esos criterios técnicos también

un plan funcional completo y ad hoc de lo que es la comarca de tolosaldea y también cómo no el hecho de que

a la comisión de salud y añadíamos algo más añadíamos también el instar al ayuntamiento de tolosa a que en colaboración con el departamento de salud encontrase y adelantase los estudios para esa ubicación e implantación de la construcción del hospital de tolosaldea

de transacción de acuerdo era una oferta precisa que creemos que no dejaba lugar a dudas en cuanto al posicionamiento y la determinación de los socialistas vascos en esta cuestión lamentamos que hayan presentado ustedes

política y que al menos espero que no sé si dará muchos frutos lo que sí sé es que han evitado ustedes al no pactar han evitado ustedes que no demos
ese pequeño paso más adelante que a usted le parecía muy bien en la enmienda gracias eskerrik asko

uste dut denok bat gatozela zeren aipatzen du que adopte las medidas necesarias el gobierno vasco para garantizar un sistema

para ello que al igual que en el resto de las comarcas sea el cien por ciento público

porque está concertada con la clínica asunción la prestación de algunos servicios sanitarios en esta comarca que como se ha dicho aquí

de todos los servicios por lo tanto hay un concierto desde un convenio específicamente con la clínica asunción de tolosa cuya propietaria es la empresa

convenio finaliza su vigencia el quince de noviembre no se

y acabará su vigencia en cinco años nosotros sí creemos que la colaboración público privada es buena y aquí se presta un servicio que es público pero mediante la fórmula del

enmienda de transacción a la que estaba haciendo una mención antes pues el objetivo es muy claro

absolutamente de que la forma de prestar el servicio por parte de osakidetza tiene que ser totalmente público nosotros creemos que

pues se puede establecer fórmulas de colaboración entre lo público

que el servicio que se preste obviamente es público

la fórmula como decía del concierto y también hay un convenio y obviamente hay unas estipulaciones

previsiones concretas en un convenio que se tienen que cumplir y por partes si una de las partes no se cumple pues obviamente

denunciable por otra parte ya se pide que se construya o se pongan las bases para la construcción de un hospital público en esta comarca y se solicita que en concreto se recoja una partida ya o que se especifique el caminar ya hacia la construcción de un hospital público en la comarca de tolosaldea

acertada la propuesta del partido nacionalista vasco va en la línea

y los acuerdos que hemos alcanzado como el último de ellos en el año dos mil dieciocho que tuvimos el último debate y en ese sentido bueno pues apoyamos que se puedan seguir adoptando todas aquellas medidas

para garantizar que las personas que vivan en esta zona tengan una atención sanitaria universal de calidad y en las mismas condiciones no solo

de la comunidad autónoma del país vasco y que se elabore ese plan funcional que concrete el tipo de recursos servicios e infraestructuras sanitarias públicas que serían las más adecuadas para responder a las necesidades asistenciales de la

por lo tanto apoyaremos como decía la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno el partido nacionalista vasco y el partido socialista va en la línea de los acuerdos que hemos alcanzado en esta cámara en relación a esta cuestión

siga garantizando que la comarca de tolosaldea los ciudadanos puedan recibir una atención adecuada y de calidad en las mismas condiciones que el resto de comarcas de gipuzkoa y del resto de osi también de la comunidad autónoma del país vasco y que se elabore

de los servicios y las infraestructuras que en su caso fuesen necesarias también creo que es algo positivo que otra cosa es que habrá que ver cuándo se pone en marcha y habrá que hacer un seguimiento

resolución que también si existen déficits en esta comarca podrían solucionarse o con una infraestructura de estas características también se podrían solventar algunos de los problemas que pudieran existir de cara a la atención a la ciudadanía

si al señor montoya se le dan diez euros pues intentará que en vez de dos tres sean para el bolsillo y que en vez de siete

el problema no es la no es que una persona intente hacer negocio de la sanidad el problema es que la administración pública lo permita orduan horri eman nahi diogu irtenbidea

todos hemos vivido yo he vivido lo de la clínica el pilar he vivido lo de la clínica la asunción he tenido lamentablemente

en mi propio cuerpo que acudir a la clínica el pilar pero estamos hablando de tiempos en los que no existía esa sanidad universal y gratuita para todo el mundo

la sanidad pública bien concretando

hay que tener muy claro que el actual modelo puede estar desfasado yo no digo que no

depende de está determinado por la decisión que adoptó este parlamento vasco cuando en dos mil ocho decidió que el sistema tenía que ser mixto

creación de la osi otra cosa es que o no se haya controlado suficientemente el contrato que se tenía puede haber múltiples opiniones al respecto pero lo que no se puede dejar en evidencia es que esto ya no sirve de ninguna manera no

porque no había posibilidades de generar unos recursos exclusivamente con la financiación pública para hacer un hospital en aquel entonces

no lo ha habido no había y hemos intentado gestionar de manera eficaz o eficiente todo es susceptible de mejora siempre evidentemente

respecto al tema de la clínica la asunción desde el minuto uno en el que este parlamento

tercera opción al plan del gobierno vasco a través del equipo del señor bengoa como consejero de sanidad y consumo en aquel entonces

en la comarca de tolosaldea fue tirar

el sistema mixto a la basura olvidarnos del tema del convenio y ha sido una cruzada contra mixto eso para dejarlo claro en segundo lugar cómo no valorar que haya una sanidad pública universal gratuita y de calidad en la comarca de tolosaldea

cómo no valorar eso cómo hacer futuro de eso ante las necesidades estamos hablando del año dos mil ocho cómo no pensar que ha habido avances que ha habido

más recursos de tipo tecnológico de tipo de respuesta en el ámbito sanitario y cómo no pensar que hoy estamos también a raíz de esta pandemia pensando en que donde hay que invertir es en el ámbito socio sanitario que también está en el acuerdo de gobierno firmado por los socialistas vascos y los nacionalistas vascos claro que hay que reforzar

de ahí que haya también un compromiso que explicó la consejera cuando nos hablaba de las líneas estratégicas del departamento y del marco estratégico se hablaba de esa nueva dirección de atención sociosanitaria eso es futuro y claro que hay que tenerlo en cuenta y el plan funcional cómo no cómo no porque estaríamos perdiendo tiempo y dinero si no fuesemos capaces de ver qué recursos hacen falta ante las necesidades que se están planteando

qué responsabilidades tenemos cada cual porque yo creo que aquí se está intentando confundir cuál es la responsabilidad de los agentes institucionales de la zona de los alcaldes y alcaldesas de la comarca de tolosaldea creo que se está intentando

creo que hay un verdadero compromiso por parte del departamento de salud en colaborar con todas aquellas estructuras que le lleven a esa implantación una vez que el plan funcional esté determinado y explicitado a ver cómo es la mejor manera y cuál es la ubicación donde implantar hospital público y los centros que hicieran falta para que esa digamos atención sociosanitaria se llevase a cabo pero no olvidemos que la responsabilidad

en manos del gobierno vasco no olvidemos que hoy la atención sociosanitaria de residencias etcétera está en manos de las diputaciones forales y también los ayuntamientos tienen su intervención pongamos a cada uno ante su responsabilidad yo comprendo lo que puede suponer para un alcalde o alcaldesa el que le vengan a contar determinadas necesidades

pero pongamos a cada cual un poco en su sitio porque si no estaremos mezclando temas y no habrá futuro pero ni para la comarca de tolosaldea

pongamos a quien está trabajando a trabajar con lo que vamos a sacar hoy que podía haber sido algo más pero ustedes han preferido una estrategia que llevan realizando desde hace tiempo

que los nacionalistas vascos y los socialistas les ofrecíamos gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

buenos días de nuevo a todos hoy volvemos a debatir sobre un tema absolutamente ideológico un tema que tiene que ver con el adoctrinamiento directo y hoy volvemos a hablar de imposición lingüística y de manipulación social un tema que ya se ha trabajado en múltiples ocasiones en esta casa y que siempre tiene el apoyo de los mismos

es aberrante y lo es porque no hay razones que no sean las dichas la manipulación de las masas para sostener tal afirmación en su mundo de color creen que por añadir los contenidos más interesantes al canal en euskera

ahora dada la gran oferta que existe en el mundo del entretenimiento audiovisual

prueben a poner por ejemplo el conquistador del fin del mundo en e te be uno verán qué rápido acaban con el programa les duele admitir que los vascos no somos tan diferentes que no hay un hecho diferencial que el español es nuestra lengua mayoritaria

el intento estéril de hacer crecer una lengua mediante el despilfarro en una televisión pública

me parece un ejercicio de irresponsabilidad terrible pero cuidado no es algo que nos inventemos en vox una importante empresa de seguimiento de audiencias certifica que en octubre del dos mil veinte e i te be tuvo las siguientes audiencias e te be dos un nueve coma seis por ciento es decir un cero coma dos más que el mes anterior

más vista ocupando exactamente el puesto número cuatro e te be uno uno coma nueve por ciento un cero coma dos menos y al mes además con un nivel de audiencia cercano a lo residual e te be cuatro cero coma siete por ciento

cero coma tres por ciento ambas perdiendo audiencia dentro de lo poco que ya se veían absolutamente nadie las veía y siguen sin verlas nadie

autonómica más cara por habitante o sea la televisión pública vasca no se puede permitir estos datos si bien es cierto que los de e te be dos son notables

si tenemos un canal que funciona por qué no promocionarlo

la pregunta es retórica porque cuando quieren difamar y manipular llegando lejos lo hacen desde la e te be dos y en español

otro dato curioso e i te be ha organizado dos debates televisados primero uno en euskera que lo vieron de media ocho mil espectadores un uno coma cinco por ciento de share el segundo en castellano que alcanzó los doscientos setenta y seis mil telespectadores

valoren ustedes los datos déjense de usar e i te be como una herramienta de propaganda y hagamos de ella un canal respetable

otro modelo de televisión es posible sin políticos al mando sin cuotas de euskera sin manipulación social

en suma que como otras muchas cosas de nuestra región sea la envidia de españa y no la herramienta de manipulación en resumen desde vox votaremos no porque con la que está cayendo euskadi no puede permitirse despilfarrar sus recursos en ideas peregrinas que no tienen recorrido

las pagamos todos los contribuyentes muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta consejeros señorías

importante celebramos san francisco javier todos y todas tenemos un javier cerca nuestro o

sobrino algún primo algún hermano o alguno de nosotros

el día de hoy porque es el día del euskera qué tenemos que decir sobre el euskera que que hace y que hará una buena pareja con el castellano y por mucho tiempo o sea que felicidades también al euskera en relación con la iniciativa

nosotros entendemos que debe de existir en este momento tal y como está el ente público

una consideración previa es decir etb debe de centrarse

en qué por ejemplo debe de centrarse en el cumplimiento de los principios que la ley que regula el ente le otorga

paulatinamente debe de centrarse en el cumplimiento de esos

y es necesario también el trabajo sobre la reforma integral del ente en el sentido de que algo no funciona bien

bastantes cosas son necesarios cambios es necesaria modernización es necesario un equilibrio perdido como lo ha reconocido también este parlamento y que en la anterior legislatura se puso a trabajar en eso para conseguir mejorar e i te be los sentidos tiene que haber una profunda reflexión tiene que haber una evaluación que aún no se ha producido en condiciones normales señora gorrotxategi su iniciativa y la transacción

serían asumibles formarían parte del desarrollo profesional cultural legal de un organismo público

plantean pero falta algo previo en relación con las cuestiones

centrarse en los principios fundadores y centrarse también

pendiente e i te be no ha estado bien gestionada e i te be se ha desequilibrado políticamente e informativamente hablando generando un pozo sin fondo generando

todos los recursos a su alcance de una manera muy poco eficiente y eso requiere otra orientación

redimensión mi grupo partido popular ciudadanos se ha centrado en una enmienda que quiere plantear superar los desequilibrios las dificultades anteriores desde luego el propósito que usted

dificultades que hoy se han convertido en deficiencias estructurales del ente público y que hay que corregirlas

sobre ellas para luego construir factores de comunicación informativos factores culturales de programación como por lo que usted se interesa pero primero hay que hacer esa labor previa que queda pendiente en relación con e i te be hay que acercar

para ello debe de suceder por la vía del interés desde luego

de la competencia cultural e informativa no en este momento en las cuestiones que se está incidiendo que es en el desequilibrio

no será como e i te be siga progresando ni siquiera en los factores culturales o en los factores de promoción del euskera

una mala gestión cada día más caótica eso sí aprovechándose de miles de millónes de euros públicos permanentemente en un pozo sin fondo

esa reflexión hay que hacerla antes para que las cosas que usted propone de potenciar una

la cuestión dialectal el hecho de promover el uso progresivo el hecho de fomentar un uso del euskera en relación con cómo hacerlo y hacer accesible

todas esas cuestiones necesitan algo previo necesitan que haya un ente público que haya una e i te be que funcione bien que esté bien gestionada

esos daños estructurales y esas deficiencias estructurales y esas dificultades desde luego con las que hoy

es esa en el aspecto de lo informativo en el aspecto de su conexión con la ciudadanía y con la población en este país además como ente público como

en esa situación yo tengo que decir que nuestra enmienda

de dos puntos que son previos además a las cuestiones

y al nuevo consejo de dirección del ente a que se cumplan los principios expresados en el artículo tres de la ley cinco barra mil novecientos ochenta y dos de creación del ente público radio televisión vasca

una racionalización del ente público en sus canales de televisión nosotros hablamos de eso porque los principios están muy claros

del ente público hablamos de los principios los medios de comunicación social de titularidad pública

informaciones muchos ciudadanos no ven que e i te be sea

no lo ven y lo han denunciado es decir que la distinción y separación entre información y opinión

e información ya deja de existir en muchos programas en muchos informativos de e i te be o sea que esos principios no se cumplen

lingüísticos en la defensa de la constitución y el estatuto sabemos que muchos programas van directamente contra la línea de flotación de la constitución y el estatuto o sea que tampoco se cumplen ahí los principios de e i te be

reconoce la constitución y el estatuto el derecho al honor

a la imagen ya hemos visto cómo e i te be utiliza programas programas para difamar para calumniar para insultar a instituciones del estado o sea que no se cumplen los principios

e i te be es que se cumplan los principios de su ley eso lo primero y segundo como segundo punto de la enmienda que es lo que este parlamento decidió en la anterior legislatura así se darán los pasos oportunos en la comisión

con carácter inmediato en la cámara los trabajos de la ponencia establecida para la reforma integral de etb

hacer esa reflexión esa evaluación en relación con etb reconocer

los principios de e i te be los principios que vienen señalados en esa ley del noventa y dos hace cuarenta años

en detrimento desde luego de la calidad es decir esas dos cuestiones son fundamentales que se cumplan los principios de la ley y que se reorganice y que se reoriente y que se reforme integralmente ese ente

su iniciativa tendrá pleno sentido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria agirre andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta y buenos días a todas y todos hoy día internacional del vascuence

la mejor correa de transmisión de transmisión en el camino hacia una socialización en un entorno euskaldun no sería el mismo si no hubiera sido por el papel tan importante jugado por e i te be

durante estos casi cuarenta años por una amplia plantilla que se encontró con la necesidad de hacer del euskera una herramienta que fuera capaz de transmitir

al ente le debemos las bases de toda una generación de periodistas que han decidido emplear nuestro idioma para comunicar valgan pues estas palabras a modo de reconocimiento a toda esa plantilla

el ochenta y cuatro por ciento se mostraba favorable a mantener la división actual de un canal en euskera etb uno y otro en castellano

solo un cinco por ciento se mostraba en desacuerdo con esa medida el informe insisto

en cuanto a las necesidades a las que se tiene que enfrentar el ente en los próximos años que yo creo que es un poco la clave del debate no podemos caer en la tentación simplista y simplificadora en extremos de trazar una línea recta y que intente unir la realidad sociolingüística de nuestro pueblo

esta fórmula ignora completamente los cambios en el comportamiento del consumo tanto en radio como en televisión e i te be como la totalidad de televisiones y radios a nivel mundial se enfrenta a un futuro cambiante que nos guste o no ya está tocando a nuestra puerta behin baino gehiagotan ganbera honetan esan den bezala

ya que el planteamiento de futuro debe ser no tanto en función de los canales como de creación de contenidos para una distribución cross media con estas palabras

ha de situarse este debate no podemos seguir pensando en clave de dos canales el futuro pasa por comenzar a trabajar sobre la idea de productos y es ahí en esos productos donde tendremos que fijar nuestro esfuerzo para impulsar el uso del euskera azken bolada honetan eitb ez da geldirik egon

otro gran paso sin lugar a dudas llamado a tener su importancia en el futuro es el de los subtítulos los estudios realizados al respecto son muy esclarecedores en cuanto al gran valor pedagógico de esta herramienta en el aprendizaje de cualquier lengua

promoviendo el uso progresivo del euskera en todos los medios y formatos de e i te be favoreciendo un bilingüismo armónico y en contacto de todas las personas con ambas lenguas

oinarrizkoa izango duena sigamos el camino comenzado en la anterior legislatura construyamos

un nuevo edificio sólido y duradero convirtamos en oportunidades los retos que se nos plantean de cara al futuro no perdamos el tren de las reformas necesarias para consolidar a e i te be como un referente público audiovisual moderno objetivo eficiente adaptado a las nuevas demandas de la ciudadanía y que tenga como uno de sus objetivos atender a la realidad sociolingüística de euskadi y fomentar la normalización del uso del euskera

no puede abstraerse del futuro que queremos para el ente intentar separar cada elemento de un debate tan importante

no podemos hacer de cada elemento del debate una herramienta para el juego político no podemos reducir el debate

con trazos simplificadores que solo parecen buscar el rédito político a corto o muy corto plazo ez gaitezela galdu eztabaida zatikatu batean inork ez du eitbk

egiteko en el texto original del grupo proponente

en euskera series documentales animación

se solicita desde el reconocimiento de lo que ya se está haciendo porque creemos desde nuestro grupo que se puede decir que la programación de e i te be es rica y variada y que con lo que respecta al euskera en los últimos meses está siendo además especialmente esperanzadora porque podemos decir además que esos programas que se han mencionado hoy o esas series que se han mencionado hoy son un paso adelante muy importante a la hora de conseguir

eta zein da adostu dugun erdibidekoaren funtsa pues no creemos que la pregunta deba ser tanto cómo fomentamos el euskera en etb

e i te be y la diferencia entre estas dos preguntas radica especialmente en dos puntos por un lado creemos que la radio televisión pública no es un fin en sí mismo

de etb no debe ser solo fomentar el euskera de puertas para adentro en la programación el reto al que se enfrenta e i te be debe

un medio una herramienta muy interesante para responder a los objetivos que tenemos como país puede ayudar a que la ciudadanía vasca conozca nuestra lengua y sobre todo

por otro la iniciativa original hablaba en todo momento de las dos principales cadenas de etb en ese sentido nosotros queríamos remarcar que etb no es solo e te be uno y e te be dos que existen otras cadenas temáticas que juegan también un papel muy importante

además queríamos decir que e i te be no es solo etb e i te be son también las radios es también la plataforma digital e i te be son también las redes sociales

a ello las generaciones más jóvenes y que son especialmente las que pueden cambiar más fácil de costumbres en lo que respecta al uso de la lengua han cambiado por completo

audiovisual y o sabemos adaptarnos o tenemos poco que hacer y es que no estábamos de acuerdo con la propuesta inicial de intercalar los contenidos entre e te be uno y e te be dos y por eso propusimos cambiarlo y no estábamos de acuerdo primero porque entendemos que no es un problema de mando la mayoría de la gente en este país en euskadi tiene sintonizadas

saben dónde tienen cada canal qué ofrece cada canal y a cuál de ellos tiene que acudir

segundo porque el perfil de la gente que sigue consumiendo

por una cuestión generacional sociológica es un perfil de gente

y entendemos que si le estamos introduciendo incertidumbre no va a ser bueno ni para ellos ni en consecuencia para e i te be eta hirugarrenik

y para terminar hablaba de la importancia que tiene el impacto que tenga impacto el contenido que se genera pero hoy en día que

a la audiencia hoy en día tenemos que explorar diferentes formatos y posibilidades

youtube son canales de influencia muy importantes entre los jóvenes y tenemos que entender qué es lo que quieren y adaptarnos a ello sin reducirnos a si un programa ha sido emitido en e te be uno o en etb bi eta zentzu horretan bukatzeko

destrozar de un plumazo las certezas que nos aporta la sabiduría de la sociolingüística después de años de investigación

una lengua es fuerte la otra lengua es más débil y ante ello y si pensamos en el papel de los poderes públicos y de la administración caben dos posibilidades

allá se las compongan y otra es intervenir si partimos

queremos proteger que queremos que amamos nuestro patrimonio cultural y lingüístico la única posibilidad la única posibilidad sensata intervenir es fortalecer la lengua que está en situación minorizada se decía que no es una prioridad cuando hablamos de e i te be que no es una prioridad

con nuestra iniciativa lo que pasa es que el objeto de esta iniciativa precisamente no es arreglar los problemas de e i te be el objeto de esta iniciativa tiene que ver con

lograr la normalización lingüística con la normalización del euskera a través de e i te be que es una de las maneras

de nuestro foco de atención los problemas de e i te be que los tiene pero lo que nosotros pretendemos el objeto de esta iniciativa no es e i te be sino el euskera a través de e i te be de la misma manera también se nos ha dicho

favor al euskera a través de la e i te be tiene muchas más posibilidades de hacerse y también es verdad es verdad

talde popular ciudadanos barrio jauna bertatik sí gracias presidenta brevísimamente desde el escaño

el euskera en este caso y para defenderlo en e i te be y la dimensión cultural que el euskera tiene o informativa

cuando un canal no sirve para que corra el agua porque se llena de cosas no pues hay que hacer algo para que el agua fluya

para que fluya la cultura para que fluya la información para todos igual para que fluya la neutralidad y el equilibrio primero hay que hacer cosas

de entorpecimientos y ese es el elemento fundamental también en favor del euskera si la vía es deficiente si el canal de promoción es deficiente

el acceso a la cuestión cultural a la cuestión

se perjudica y se empobrece y se desequilibra y eso es lo que no queremos por eso primero queremos adoptar una actitud previa arreglar lo que no funciona muchas gracias

en primer lugar me gustaría agradecer el esfuerzo que hemos realizado en estos últimos días al señor díez del partido nacionalista vasco y al señor angulo de elkarrekin podemos izquierda unida porque al final bueno pues hemos llegado a un acuerdo

ya enriquece en sí el acuerdo y hay que mirarlo en positivo

sobre cómo impulsar el euskera a través lo ha dicho también la portavoz

a través de una herramienta concreta que es e i te be

de varias de las intervenciones es una enmienda a la totalidad de e i te be o bueno otras cuestiones totalmente diferentes que no tenían nada que ver

al tema que se me pide del que hable porque si hay que hablar de e i te be no es el momento desde luego pero cada vez que ha sido necesario

o las cuestiones que estaban en torno a e i te be no eran o no nos parecían adecuadas los socialistas nunca nos hemos callado en esta misma legislatura hemos tenido oportunidad de criticar y hablar seriamente sobre ciertos contenidos que podría tener o había emitido la cadena pero también es verdad en trayectoria en estos casi cuarenta años también tenemos que reconocer todas las aportaciones que el ente ha realizado ha realizado y sobre todo y en este caso porque es el tema que trata las aportaciones que ha realizado al euskera un euskera batua que en su

desde luego se ha ido construyendo de una forma bastante estructurada gracias a tener herramientas como ha sido e i te be y luego

una última reflexión muy rápida no podemos hacernos trampas al solitario o sea no podemos

no podemos hacer un vínculo directo entre la realidad sociolingüística y la audiencia no no es que vivimos un mundo de turbulencias dentro de lo que son los medios de comunicación de lo que son los productos de lo que son los canales el análisis tiene que ser mucho más profundo y yo creo que la ciudadanía lo que nos pide a nosotros aquí es que seamos lo suficientemente maduros

que aquí hay mundo que está cambiando y que son necesarias reformas que son necesarias reformas yo no sé

es una cosa clara y es que todos tenemos o buena parte de nosotros tenemos la voluntad de dos cosas primero o el deseo de dos cuestiones primero hay que cambiar e i te be hay que meterle una reforma y lo segundo ya no es el momento de los dichos

veremos cómo se articula me imagino que insisto no es el tema ni el momento ahora de hablar de la parte más estructural de e i te be

que esa es la voluntad y en ese debate que es lo que intentaba decir antes y en ese debate es donde tenemos que integrar las herramientas necesarias para saber cómo impulsamos el euskera posiblemente decía y vuelvo a insistir no tengamos que volver o no tengamos que caer en el bucle de los canales y la idea de los canales porque hoy en día nadie consume o lo he dicho también

más jóvenes de cuarenta y cuatro años donde yo justo me sitúo en el límite ya no consumimos la televisión sentándonos en la sala de nuestra casa y tirándonos tres horas

es necesario que seamos conscientes de esa realidad porque en esos productos que tendremos que ofrecer es donde tendremos que integrar la visión del impulso del euskera y

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio sí que

o por lo menos saber en qué consistía su enmienda porque en el primer punto ustedes hablan de redimensión y racionalización del ente en sus canales y me reconocerá que

podemos entender por una parte que ustedes lo que quieren es lo mismo que se pedía en el texto original que fuera que el contenido en euskera se intercalara entre los dos canales pero me temo que no es eso

lo que nosotros entendemos que ustedes quieren que es menos inversión menos estructura y en definitiva una radio televisión pública vasca

eso es lo que ustedes quieren si es el segundo punto ya le digo no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y además no era el punto del debate no era el punto del debate estábamos hablando como ya le han dicho de cómo fomentar el euskera bien en etb y bien por medio de e i te be por lo tanto le digo lo mismo que le digo

que ustedes nos vienen a hablar de la ponencia de la vuelta a los trabajos

pero es que no era el punto del debate estábamos hablando del euskera por lo tanto no nos sorprende tampoco le tengo que decir que no nos sorprende que ustedes cuando se habla de e i te be nos

porque cuando se habla de sanidad en este parlamento ustedes dicen no el dinero de e i te be

de e i te be estamos hablando de cooperación al desarrollo que a usted y a mí nos ha tocado alguna vez y usted el dinero de e i te be es que parecen ustedes los señores de euskal herria bildu lo único que ellos lo hacen con el tren de alta velocidad y usted lo hace con e i te be

abiapuntua ez dela egia esaten duzue como los niños están en casa han perdido el contacto con el euskera porque los centros están cerrados no mira los centros no están cerrados los centros no han sido focos de contagio los niños no están en casa

los niños no están en casa los niños están en clase los centros no han sido focos de contagio los centros están abiertos y por lo tanto lo que usted nos propone podría ser

en esta estrategia que ustedes tienen de dibujar un escenario catastrofista a lo mejor a ustedes les gustaría primero dirían que se cierren después dirían que se abran pero bueno pues eso no es así